faboritismoa klientelismoa adiskidekeria viajes con las empresas adjudicatarias tráfico de influencias

la comisión de investigación que se puso en marcha en el ayuntamiento

graves responsabilidades políticas en las personas del señor

el alcalde que en un momento determinado es recolocado por el partido nacionalista vasco en metro bilbao y de jon exconcejal de deportes todas estas cosas las puso de manifiesto la investigación puesta en marcha

hay ciertamente antecedentes también parlamentarios iniciativas varias presentadas por upyd preguntas interpelaciones comparecencias algunas de las cuales nunca pudieron llevarse a la práctica y alguna proposición no de ley la última proposición no de ley que hemos rebatido en relación a esta cuestión data

pedíamos básicamente dos cosas la destitución del señor arruebarrena como director gerente de metro bilbao consecuencia de las responsabilidades políticas que tenía que tuvo en el tema pinosolo y por otro lado la reprobación de la consejera por su actuación

y sus respuestas dadas en relación a esta cuestión en esta cámara en este parlamento y en las comisiones respectivas lo cierto es que como consecuencia de aquella iniciativa el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista firmaron una transaccional para

el voto favorable de aquello que el resto de grupos pedíamos qué era lo que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi firmaron para impedir que esta iniciativa pudiera salir adelante lo que vinieron a decir fue básicamente lo siguiente no vamos a votar a favor de esta iniciativa vamos a llevar este asunto a la comisión para ver efectivamente qué es lo que dice la comisión ética y qué es lo que dice la comisión ética dice la comisión ética en respuesta recientemente recibida que no es competente para analizar la situación del señor

y este es un fraude político monumental el fraude político cometido por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi que deciden llevar este asunto a la comisión ética a pesar de que sabían perfectamente que la comisión ética no era competente

auzia berriro ere parlamentura ekartzea erabaki genuen qué es lo que se ha puesto de manifiesto y lo que a día de hoy evidentemente no ha prescrito

la petición que hoy volvemos a realizar que es la destitución de eneko arruebarrena como director gerente de metro bilbao la mala gestión el derroche del dinero público

la recolocación del señor arruebarrena en metro bilbao para huir de sus responsabilidades políticas en leioa su negativa también a colaborar

su negativa a responder a los grupos parlamentarios de la comisión de este parlamento a donde por cierto algunos grupos de esta cámara impidieron que otras personas relevantes acudieran a contar lo que sabían en concreto jon loizaga exconcejal de deportes

pedimos por lo tanto comparecencia sin embargo algunos grupos impidieron que esas comparecencias pudieran desarrollarse por todo ello y habida cuenta la respuesta de la comisión ética pedimos nuevamente la destitución de eneko arruebarrena y la proposición planteamos por lo tanto por aclarar no es que pretendamos traer un asunto ya debatido sino que traemos un asunto

el dictamen de la comisión ética porque en la última ocasión en que este asunto se debatió el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi decidieron llevarlo a aquella

ética ha dicho que no es competente por eso en este caso no hemos incluido la reprobación de la consejera

en la destitución del señor eneko arruebarrena sobre él pesan responsabilidades políticas mala gestión derroche

a colaborar con la comisión de investigación del ayuntamiento de leioa negativa a colaborar en los trabajos parlamentarios durante su comparecencia en la comisión parlamentaria todo esto efectivamente volvamos a traer este asunto supongo que el partido nacionalista vasco y especialmente el partido socialista de euskadi no tendrán ya ningún inconveniente para

de su destitución no puede ser que a determinados representantes políticos especialmente si tienen el carnet del partido nacionalista vasco se les perdone todo no puede ser que se les recoloque en determinados puestos para poder huir de sus responsabilidades políticas esto es clientelismo

esto es enchufismo no puede ser tampoco que la consejera se negara permanentemente a explicar todo esto no puede ser que el propio señor eneko arruebarrena se riera de todos nosotros cuando compareció en la comisión

que diría evidentemente volvemos a presentar esta propuesta y para ello pido el voto del resto de grupos gracias eskerrik asko maneiro jauna

mucho hemos hablado ya sobre el caso pinosolo hemos debatido también sobre todos los delitos que se le imputaron al ex alcalde pero queremos repetir que ni arruebarrena

ni mucho menos más que le pese al pnv lo que ha sucedido y hay que dejarlo claro es que tres de los cuatro delitos por los que fueron imputados han prescrito según la juez el delito que no ha prescrito por ahora

para que así suceda es el de prevaricación quizá un delito menor para el pnv

en sus manos que pueda pasar algo o que finalmente acabe no sucediendo nada en esta cámara en relación al caso pinosolo

la corrupción sale muy barata a muchos partidos políticos demasiado

responsabilidad alguna de los gestores sobre lo que han realizado en el tiempo que han sido máximos responsables de la gestión institucional así se puede arruinar un estado vender empresas públicas estratégicas favoreciendo a sus amigos privatizar cajas llevarse dinero en sobres o llevárselo a través

se mira para otro lado si los bancos perdonan prestamos a determinados partidos políticos y no pasa absolutamente nada mejor dicho

y ante esta realidad la contraria el endurecimiento del código penal para castigar la protesta social esa es la realidad en la que vivimos políticos

repito por un lado pretendemos que ninguna persona que ha cometido por lo menos una nefasta gestión de lo público y que ha favorecido los intereses de las empresas pueda ser seleccionado para gestionar otra empresa pública aunque su trabajo el de cuadrar los horarios de los trenes con una puntualidad suiza que es lo que preocupa a la consejera

y por otro lado introducimos otro punto que mantiene lo que ya defendimos en junio pasado en el último debate que tuvimos en relación a este tema

en aquel pleno posterior a las elecciones fuimos testigos preferentes de cómo los intereses de los partidos políticos se situaban una vez más por encima de los intereses de la ciudadanía así vimos como el representante del pse cambiaba la postura que había mantenido

y firmaba con el partido nacionalista vasco el acuerdo por el que no se exigía ninguna responsabilidad al gobierno para destituir a arruebarrena y tampoco se le reprobaba a la consejera oregi que recordemos

no dio ningún tipo de información en dicha comparecencia y se limitó hablar

del ex alcalde en metro bilbao por cierto la consejera nunca supo dar ningún solo dato de por qué arruebarrena era un buen candidato para la gestión de metro bilbao

hasta el día en el que fue elegido a dedo por el partido nacionalista vasco ante la actitud de la consejera el propio portavoz del pse anunció que sus actos tendrían consecuencias

relajaron esa demanda hasta hacerla desaparecer como soy persistente

por su actitud ante el caso pinosolo sin olvidar que podríamos reprobarla por multitud de causas

mandato parlamentario que nunca ha respetado en relación a los montes de vitoria así teniendo en cuenta que completamos la iniciativa inicial que aquí se presenta y que el proponente si es coherente y espero que lo sea estoy seguro de que no tiene ninguna pega hoy en votar nuestra enmienda ya que mejora la suya incluso recupera la esencia del debate del pasado junio

de resarcirse en este asunto y volver a su posicionamiento inicial incluso el pp manteniendo el discurso que ha venido sosteniendo hasta hoy puede votar nuestra iniciativa

de aquellos de sus afiliados que han utilizado las puertas giratorias para recolocarse

hechos como los de contrataciones previas a las adjudicaciones viajes con dinero público presiones y amenazas

izen abizenik ez dutenik queda en nuestras manos que en política haya responsabilidades o no las haya y que quienes la hagan

o por lo menos no sigan viviendo de lo público por ser de un determinado partido o de otro

es cierto que hay nuevos y significativos hechos desde entonces pero hechos que desde nuestro punto de vista lo que ratifican es la procedencia del rechazo que se dio en esta cámara a su iniciativa el pasado día once de junio más que para volver a plantearse en primer lugar

el acuerdo ocho barra dos mil quince de ocho de julio de la comisión de ética pública que ante la consulta planteada por esta cámara resuelve que ni por requisitos de carácter subjetivo ni temporales la comisión debe pronunciarse al respecto y por otro lado

calificado el pasado viernes por el señor maneiro de auténtico despropósito lo cual

nos sorprende y también escuchándole en el primer punto de este pleno también nos sorprende que es escrupuloso para algunas

califica esas resoluciones como auténtico despropósito

la justicia es el órgano supremo y cuando no amparado en su aforamiento que tantas veces parece que quiere repudiar de él y luego

acuerda archivar las diligencias de investigación que en su día incoó a resultas de la denuncia presentada el uno de diciembre del dos mil catorce por el partido popular de bizkaia

como algún medio de comunicación y también algún partido político ya lo hemos visto han querido proyectar de manera tendenciosa y sesgada es decir hay dos formas actuar de oído se puede perdonar

en un político entendemos que no es de recibo gaia bertan behera uzten da izan ere ez da balizko delituen

zentzuei dagokienean ere la investigación realizada por la fiscalía provincial con la policía nacional como policía judicial no ha sido la ertzaintza la que ha funcionado como policía judicial no ha sido cerrada de raíz

ya que se extendió durante más de ocho meses practicándose múltiples pruebas de todo tipo y literalmente dice la fiscalía por razón del

no quedan acreditados indicios suficientes para continuar la investigación o presentar denuncia por lo que se acuerda el archivo de las diligencias de investigación

hoy hubiera tenido lugar al inicio de la instrucción no tras ocho meses de prolijas e intensas investigaciones

en el decreto de la fiscalía así que dicho esto los dos argumentos de peso que le quedan al señor maneiro para seguir insistiendo en este tema son los mismos que mantenía en el pleno del once de junio tal y como se recoge en la justificación

y el dictamen de la por usted llamada comisión de investigación desarrollada en el ayuntamiento de leioa respecto al primero de ellos dice que hay una resolución del tribunal de la competencia que sanciona al consistorio y lo repite a pesar de que se lo dijimos claramente en el pleno del once de junio esa resolución sanciona a dos empresas

autónomos dependientes del ayuntamiento cuyo máximo responsable y representante en su caso sí sería el alcalde se lo dijimos pero como dice el lehendakari parece que no escucha porque se lo dijimos claramente tiene la resolución

en este momento para que en su segundo turno de intervención nos lea literalmente dónde dice que se sanciona al consistorio en el expediente cinco barra dos mil doce

donde se resuelve este expediente díganos en cuál de los once apartados de esta resolución

o a algún organismo autónomo dependiente del mismo por favor léanoslo como suele decir usted en esa terminología grandilocuente es absolutamente inaceptable

como este en algo que es totalmente falso berriro ere maneiro jauna zorroztasuna eta ardura eskatzen dizugu y respecto al otro argumento en el que también parece el partido popular y bildu el único que realmente les queda son unas conclusiones de una ponencia de investigación

ya que no se podía legalmente y tuvieron que inventarse hasta ese nombre

y que tal y como les dijimos en el pleno de once de junio cumple con todos los criterios contrarios a lo que debe ser el concepto de la justicia legalidad

estamos ante unas conclusiones políticas parciales interesadas y partidistas

lo cual es legítimo pero siempre que se desarrollen con unas mínimas garantías legales y procedimentales y aquí

ya nos han dicho que han leído las conclusiones lo que no se si saben o han leído

por el secretario municipal y por el secretario de la ponencia de investigación en la que se pone de manifiesto la más que dudosa legalidad

composición funcionamiento y atribuciones por tanto tenemos dos elementos importantes unas conclusiones políticas parciales interesadas y partidistas de una ponencia

por los principios de legalidad e imparcialidad en aras de garantizar el interés público ya sabemos porque lo reiteraron ustedes sobre todo upyd y bildu

dijeron claramente los hechos están demostrados los responsables están señalados

con ese planteamiento está más que claro cuál es su posicionamiento nuestro grupo parlamentario y nuestro partido tiene claro que hay que poner todos los medios posibles para acabar con la corrupción política

pero también que hay que respetar la presunción de inocencia para todas las personas para todas no solo para las que nos interesan y establecer todas las garantías procesales necesarias para evitar adoptar medidas injustas ilegales irreparables

y en esta línea iba la iniciativa que se aprobó en juntas generales de bizkaia iniciativa socialista

y por coherencia con ello con lo mantenido desde el principio hasta este momento por nuestro grupo volvemos a plantear nuestra enmienda en el mismo sentido que se proceda a apartar a los cargos públicos a los cuales se les incoé auto de apertura de juicio oral por delitos ligados con la corrupción que es cuando un órgano judicial

y todo ello en aras a buscar un equilibrio entre la presunción de inocencia y el reforzamiento de la transparencia en la lucha contra la corrupción

la prescripción esos tres de los cuatro delitos que han prescrito y si no será en el segundo turno pero sí que para que tenga oportunidad de replicar y no me diga que lo utilizo en el último turno creo que los que en este punto se van a juntar antes

le achacaba a esa bancada que hablasen de corrupción política

que bueno entonces nosotros lo que venimos a decir y se lo dijimos en el pleno de once de junio es que la corrupción política que es muy grave y que por supuesto como hemos dicho hay que combatir y atajar hay otra corrupción peor que es la corrupción humana o moral y de eso como le dijimos en ello porque todos conocemos ustedes pues tienen bastante mochila al respecto como tengo tiempo voy a centrarme

la fiscalía como primera criba la fiscalía descarta a la luz de la investigación

con respecto al de cohecho ni siquiera es tomado en consideración de inicio falta de concurrencia respecto a los delitos de revelación de información privilegiada y desviación de caudales públicos a uso público

del concurso de funcionarios públicos lo que manifiesta que en modo alguno ha quedado acreditado

respecto al segundo por razón de los famosos viajes para examinar instalaciones deportivas no se entra siquiera a valorar su concurrencia por considerarse prescrito este sí que se considera prescrito entonces es evidente que ante

que hace unas acusaciones gravísimas aquí están las tipologías donde pueden encuadrarse ha habido unas investigaciones durante más de ocho meses por la fiscalía y creo que

es claro y contundente y tiene que cerrar este tema de una vez por todas besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

es verdad volvemos a debatir hoy aquí una iniciativa relativa al caso depinosolo nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda porque estábamos

que es verdad que se votó en el anterior pleno pero que finalmente no se aprobó porque lo que salió adelante fue una enmienda transaccional

el nombramiento del señor arruebarrena a la comisión ética a fin de que esta emitiera dictamen pues dos cuestiones quiero poner de manifiesto a este respecto y la primera ya se ha dicho aquí y nos parece una maniobra absolutamente falaz

a la comisión ética para que emita un dictamen a sabiendas de que al no ser un cargo del gobierno y haber ocurrido anteriormente no va a tener por qué

se lee el debate anterior el propio señor zorrilla en ese debate ya lo decía ya lo decía

sabíamos todos lo que iba a suceder fue una maniobra de distracción en toda regla

y esta es la segunda cuestión a la que me quiero referir como yo dije en aquel pleno sin tener

dije entonces cuál iba a ser el dictamen de esa comisión ética y nosotros desde este grupo mantenemos la petición de que el señor arruebarrena no siga al frente de la gestión de la empresa pública metro bilbao

expusimos en ese pleno y que nada nada tienen que ver con las posibles responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrir el señor arruebarrena y sabía perfectamente

la resolución el decreto de fiscalía como hizo el señor erkoreka el otro día y a este respecto también le quiero poner

este es el decreto lo tengo aquí y las resoluciones hay que leerlas bien y hay que leerlas enteras

y a dicha resolución es verdad que se valora la comisión de posibles tipos penales y yo lo tengo aquí y se lo puedo leer después de los cuales

dice que no se puede entrar porque están prescritos les ha salvado la campana al señor arruebarrena le ha salvado la campana

hechos a los que no concede relevancia penal es verdad pero que están siendo analizados por otras instancias judiciales y que demuestran irregularidades por ejemplo

la resolución de competencia y admite que ha habido flujo de información estratégica en las empresas y que ello afecta al proyecto central también

que ha habido viajes conjuntos de responsables políticos del ayuntamiento de leioa con representantes de la empresa

es el que dice que no puede entrar precisamente por prescripción pero que no se explica ese viaje

y la existencia de una grabación de un funcionario que pone de manifiesto que los contratos se concedían por afinidad política además de abrirse una pieza separada por amenazas luego la resolución no es para sacar pecho señor zorrilla precisamente porque ya le digo les ha salvado

y porque deja patente irregularidades habidas en la gestión de este deja patente que ha habido amiguismo y nepotismo y yo dije que eran esas irregularidades esas irregularidades la nefasta gestión la que motivaba la petición de que no siguiese en el cargo el señor arruebarrena al margen

esas responsabilidades penales existiesen o no porque existían responsabilidades políticas

esa ponencia de investigación verdad que aunque haya resoluciones que digan que no estaba bien constituida ni sus miembros

y la verdad es que las conclusiones no dejaban lugar a dudas sino más bien todo lo contrario concluían que habían existido

de fiscalía demostraban que había habido decisiones en el mejor de los casos equivocadas y que la gestión política y económica que se había llevado en este asunto por parte del señor arruebarrena y por parte del equipo de gobierno había sido despropósito

como dije en ese momento un polideportivo fallido un polideportivo fantasma que antes de poner la primera piedra ya casi costó dos millónes de euros a todos los vecinos de leioa a lo que hay que unir también lo

tuvieron un sobreprecio importante luego casi cuatro millónes de euros tres millónes

que tienen que pagar todos los vecinos por una gestión económica nefasta y con estos antecedentes de brillante gestión económica la primera pregunta que nos hacíamos

y de forma adecuada una entidad que maneja un presupuesto como el de metro bilbao más allá de que haya conseguido mejorar la puntualidad y el aumento del números de viajeros que parece ser el único mérito que tiene

luego también a la hora de ver su capacidad hay que reflexionar sobre cuál ha sido

como responsable político una actitud arrogante que ha demostrado un nulo respeto institucional no dando la cara

de su propio ayuntamiento y cuando compareció

por la situación y además tampoco dio explicaciones en todo este proceso ha habido cuestiones muy serias y muy graves muchas como decía recogidas en ese

porque como digo la figura jurídica de la prescripción se ha impuesto funcionarios amenazados por responsables políticos que continuaron en su cargo con la aquiescencia del señor arruebarrena este gobierno

la excelencia la eficiencia la imparcialidad la transparencia la objetividad y la ejemplaridad como valores que tienen que ser consustanciales

lo compartimos pero mire cuando uno es nombrado para un puesto normalmente se tendría que ver

y ni la excelencia ni la eficiencia ni la imparcialidad ni la transparencia ni la objetividad ni la ejemplaridad precisamente son atributos

de la gestión del señor arruebarrena al frente del ayuntamiento

y contenidos en el código ético que se aplica en la forma que le conviene a este gobierno y cuando le conviene a este gobierno

la gestión de este caso es absolutamente contraria de principio y fin a lo que es el espíritu y la letra del código ético

que el código ético para este gobierno es propaganda política pura propaganda política y postureo no es más que papel mojado

éticas y de conducta no deben de ser propaganda señores del partido nacionalista vasco deben ser una máxima en la actuación eficiente de la gestión política y además de una necesidad para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones

los datos objetivos ponen de manifiesto que independientemente del decreto de fiscalía blandido aquí por usted el señor arruebarrena realizó una gestión absolutamente inadecuada siendo benévolos

inadecuada y contraria a la ética y por eso

lo mismo que dijimos aquí en el pleno anterior es esa gestión inadecuada y contraria a la ética
la que lo invalida para seguir al frente de metro bilbao eskerrik asko llanos anderea

del parlamento al juzgado y cuando este no nos da la razón vuelta al parlamento así que los socialistas nos vamos a entretener poco

a dónde quiere dirigirse tenemos una posición clara presidimos una comisión de investigación en el ayuntamiento de leioa que llegó a unas conclusiones pesar de que no le gustan al señor zorrilla muy claras

para la construcción del polideportivo está escrito así y tiene nuestro voto

saltándose el consenso con los demás grupos pero en fin esa es su responsabilidad

los tipos penales aplicables según esa denuncia de partido

porque hubo una mala gestión y si no hay responsabilidad penal le voy a leer literalmente el último párrafo de esa resolución judicial es por prescripción dice así

faltos de explicación alguna los hechos pudieran suponer una desviación de caudales públicos a usos privados que permiten la imputación del artículo cuatrocientos treinta y tres del código penal puesto que en ese tipo penal encajan los gastos con falta de justificación de la finalidad pública

o conllevan un manifiesto abuso de los fondos públicos sin embargo la fecha de los hechos y la pena de multa y suspensión prevista para este delito a la fecha de los hechos

impide continuar su investigación por prescripción luego es por prescripción por lo que no se ha seguido investigando

del asunto y en este escenario se pone de manifiesto una vez más la necesidad de que la ley de transparencia en el sector público que está a punto de llegar a este parlamento

mucho más claro y contundente que el que aparece en el borrador de dicha ley porque en efecto que no se puedan establecer responsabilidades penales bien por prescripción

no puede dejar sin reproche efectivo la mala gestión de un dinero que es de todos los ciudadanos nosotros mantenemos lo hicimos entonces y ahora también que el señor arruebarrena fue

un mal alcalde y sobre su gestión en el metro

la verdad es que no tenemos opinión porque la consejera efectivamente solo nos cuenta que los trenes llegan puntuales dicho esto es responsabilidad de este gobierno del gobierno vasco decidir en manos de quien pone a dirigir las empresas y sociedades públicas que dependen de este ejecutivo y lo que volvemos a reclamar

que ya ha tardado en llegar debe establecer los criterios de gestión de ese sector público vasco y sancionar las actuaciones que se alejen del interés público y ya llega ese debate a este parlamento y es el sitio donde tenemos que resolver de una vez

el caso del mal uso de recursos que a todos nos merecen reproche y corrección por eso no vamos a respaldar ninguna de las propuestas presentadas ni la que pretende provocar una situación no tasada cuando ahora está en nuestra mano en la de los parlamentarios establecer todas las prevenciones que consideremos convenientes

si lo que quiere alguno es ventilar rencillas entre partidos que lo haga

en que lo que está pasando y lo que ha pasado no pueda volver a producirse y eso tenemos en nuestra mano hacerlo en este parlamento eskerrik asko pastor jauna

lo que es la reprobación de la consejera no hemos querido incluirlo en esta iniciativa porque es un asunto que ya se debatió en su momento saliendo al paso el grupo socialista y ayudando al partido nacionalista vasco a que aquella iniciativa no saliera adelante y sobre esta cuestión digamos que no ha habido mayor

por eso no hemos querido incluir este asunto en la iniciativa recordamos por lo tanto perfectamente aquella iniciativa

el partido socialista y el partido nacionalista vasco llegaron a un acuerdo absolutamente vergonzoso y vergonzante por el cual decidían llevar este asunto a la comisión ética sabiendo perfectamente que la comisión ética no es competente

asunto qué le parece que el partido nacionalista vasco pretenda llevar

ética cuando sabe perfectamente que no es competente a esto como lo llama usted consiguió efectivamente engañar al partido socialista como en tantas otras ocasiones pero al resto de grupos no ha conseguido engañarles y puesto que tenemos ya la respuesta efectiva de esa comisión ética por eso y puesto que se mantienen las razones para pedir la destitución de arruebarrena hemos decidido este asunto a esta cámara en relación al escrito de la fiscal evidentemente tenemos nuestra propia opinión nos parece

un auténtico despropósito nos parece que el escrito de la fiscal más parece un alegato de la defensa que un intento de arrancar un proceso que busque

ignora que arcain en susdeclaraciones ante la autoridad de la competencia hasta en cuatro ocasiones afirma que el famoso plano o intercambio de información lo recibió del ayuntamiento argumenta la más que dudosa prescripción de los delitos es decir cuándo se han producido los hechos supuestamente delictivos y el tiempo transcurrido para que hayan prescrito no se fundamenta por lo tanto una cosa es que respetemos la decisión de la juez la fiscal

sus argumentos o su falta de argumentos no compartimos el escrito de la fiscal y efectivamente pensamos que hay que seguir investigando pero en todo caso al margen de que tenga que seguirse investigando este asunto

hay responsabilidades políticas y usted vuelve a equivocar otra vez los términos no sabe distinguir las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales no sabe distinguir este asunto aquí estamos hablando de las responsabilidades políticas y las responsabilidades políticas se mantienen

el resto de grupos nefasta gestión información privilegiada derroche de dinero público viajes con dinero público en fin

del ayuntamiento de leioa que señaló irregularidades graves y varias y evidentemente tenemos la recolocación de esta persona en una empresa pública a iniciativa del partido nacionalista vasco es decir a una persona que es responsable de irregularidades

lo que hace es se le premia el partido nacionalista vasco premia

por sus irregularidades cometidas y por su mala gestión esta persona que se negó a comparecer ante la ponencia de investigación esta persona que a los meses se negó a dar ningún tipo de explicación en la comisión parlamentaria de este parlamento vasco a esto ustedes cómo lo llaman esto les parece normal le premian ustedes en un ejercicio claro de enchufismo y de amiguismo

por el gobierno de sus amigos recolocan a su gente

y resulta que ante estos hechos aquí no somos capaces de conformar una mayoría parlamentaria que denuncie estos hechos y que ponga al partido nacionalista vasco porque efectivamente como acabamos de comprobar el partido socialista de euskadi vuelve otra vez a salvar al partido nacionalista vasco el señor pastor

que ha habido amiguismo que ha habido clientelismo que ha habido irregularidades que ha habido nefasta gestión que ha habido información privilegiada lo dice así y sin embargo luego lo que hace es votar en contra de esta iniciativa así no hay manera señores socialistas de

del partido nacionalista vasco otra vez vuelven a pactar con ellos para salvarles la cara ciertamente triste se tapan otra vez sus vergüenzas en todo caso insistimos una cosa son las responsabilidades políticas

están perfectamente determinadas y por eso mantenemos nuestra iniciativa para que se destituya cuanto antes a esta persona del cargo que ahora dispone y evidentemente nos reservamos el derecho a llevar a cabo nuevas actuaciones judiciales

es curioso que volvamos a hablar en estos términos y sobre todo que se esté intentando traer el debate

juzgar aquí o por lo menos poner los medios para que así pueda ser es la responsabilidad política evidentemente que existe una responsabilidad política era un gestor de lo público y existe una responsabilidad política de sus actuaciones actuaciones que por lo menos

que no fueron adecuados o es su forma

la de reunirse con los empresarios previamente a unas adjudicaciones usted hace esas cosas usted se reúne y viaja con empresarios

pero no en un viaje personal sino con el ayuntamiento en un viaje político un viaje de trabajo usted suele hacer esas cosas entiendo que no

usted cree sinceramente que no hay ningún tipo de responsabilidad política en un ex alcalde que no solo tiene unas relaciones preferentes con unas empresas para la construcción y la posterior adjudicación de un proyecto

acaba pagando facturas previamente por los trabajos realizados previamente a las adjudicaciones usted cree que no hay ningún tipo de responsabilidad política cuando el que era concejal de deporte hablaba directamente con las empresas

esas instalaciones para el proyecto usted cree que no estaba ya todo preparado para que fueran unas empresas las que se llevasen

existe un problema y el problema es cómo se hacen las cosas si eso es lo normal las cosas no se hacen bien uno porque eso se llama clientelismo político

que el clientelismo político si no es delito o ha prescrito o no hay ningún problema el problema

tiene usted y cuide su moral también porque eso es un problema con el dinero público por lo menos yo y esa bancada tenemos claro que no se juega

ustedes parece que no tanto al menos cuando viene aquí a defender

lo realizó bastante mal y eso es lo que nos ha ocupado el debate pero el debate real venía a ser otro o al menos así el proponente lo quería así

a que esa persona sea destituida de metro bilbao y es evidente con todo esto que le he preguntado y que usted creo que no lo ve como normal en lo que sería la administración o gestión de una institución pública

puede estar liderando un proyecto público usted pondría la mano en el fuego por esa persona la pone de hecho

a día de hoy la pone sin ningún tipo de rubor ahí está otro problema que seguramente tiene el partido nacionalista vasco lo que se pide aquí es que los representantes que están en el consejo de metro bilbao pidan que esa persona deje

y esa es la gran apuesta que se hace hoy aquí se ha dejado de lado

que la consejera también por lo menos sea reprobada a nivel político porque algo que decir también tendrá este gobierno y no únicamente la bancada o el partido que sustenta al gobierno que ya lo ha dicho bastante claro

y defienden las puertas giratorias y el clientelismo pero el gobierno algo también ha dicho sobre eso y nos lo dejó claro en las comisiones no nos dio ni una sola información y no solo eso si no que además una y otra vez venía a contarnos lo bien que funcionan los tiempos en metro bilbao

del resto de parlamentarios legítimas por otra parte ya que este gobierno es el que nombra o tiene cuatro

de metro bilbao y nombra al director la consejera se salió por la tangente

y mientras tanto pues una vez más el partido socialista de euskadi se pone de perfil y deja pasar otra oportunidad de dejar claro que por lo menos aquí en euskadi el clientelismo las puertas giratorias la corrupción etcétera etcétera no salen gratis o por lo menos

luego en la explicación general del decreto nuevamente pues le daré respuesta pero sí que quiero

utilizó y de manera totalmente injusta desde nuestro punto de vista en el pasado pleno de política general hacia el lehendakari

respecto a las conclusiones de la fiscalía aquí se han hecho distintas interpretaciones unos de oído otros porque como parte denunciante tienen la resolución y yo creo que he hecho una síntesis de lo que la resolución dice y

descarta unos delitos o unas conclusiones que vienen de la ponencia muy graves con unos hechos muy graves delito de prevaricación malversación de fondos públicos

información privilegiada y respecto al segundo es decir el de los viajes no se entra ni siquiera a valorar su congruencia por considerarse prescrito es decir

la resolución porqué se cierra literalmente porqué se cierra el asunto porque de las diligencias practicadas

por lo que se acuerda el archivo de las diligencias de investigación respecto al partido popular

nos quiera dar lecciones de esta materia y se quiera erigir

tiene la misma credibilidad que escuchar a la señora secretaria general decir que la retirada de la propuesta

la puntualización es decir que la credibilidad de su partido especialmente en esta materia es cero

porque pierde toda la credibilidad y la confianza de la ciudadanía cuál es su objetivo su objetivo será intentar ensuciar a los demás para tapar sus vergüenzas pero nuevamente

es de difícil o imposible cumplimiento ya que difícilmente se puede tapar el cielo con dos manos a ustedes si que no les salva ni la campana señora llanos

manchando el nombre de una persona todavía más y cebarse con esa persona no iba a entrar en ello pero creo que merece la pena destacarlo

horrorosa pues bien a treinta y uno de enero cuando deja el cargo

es decir arcas municipales sin deuda y con más de veinticuatro millónes libres

si eso para usted es nefasta está en su derecho parece que los del partido popular lo hacen mejor pero los datos son los datos y luego hay un juez un juez que este sí que juzga la responsabilidad política es la ciudadanía y no hace mucho no hace mucho creo que fue el veinticinco de mayo la ciudadanía se pronunció y se pronunció en leioa también se pronunció en leioa y ante una gestión tan mala como la que ustedes quieren poner aquí el pnv ganó en todos los barrios en todos los colegios y en todas las mesas electorales el partido popular perdió el treinta y cinco por ciento de los botos en leioa si tan mal lo hacía el pnv es que la gente es tonta la gente es tonta yo creo que no yo creo que no que la gente sabe lo que hace

es lo que coloca a todo el mundo en su sitio quién mezcla la responsabilidad política y la penal quién quiere judicializar la vida política señor maneiro

los hechos y los datos objetivos ahí están si alguien tiene clara la diferenciación somos nosotros quiénes

sin acudir a la vía judicial cuántos asuntos siguiendo el criterio que ustedes mantienen

proyecto de descarga etcétera etcétera el pnv no hace eso no juega así y aquellos otros que a la mínima y con el único objetivo de dañar al adversario político a la mínima se dirigen a los juzgados es lo que tiene es lo que tiene que cuando le salen mal las cosas

denunciados por bildu en los cuales finalmente la resolución judicial ha sido de archivo dígame un asunto en el que denunciado por bildu el pnv o cargos del pnv ha sido condenado

que hay que reservar y preservar la separación de poderes la presunción de inocencia

se ha dicho en esta cámara portavoz de eh bildu que ante casos de corrupción no pasa nada y sí pasa pasa que si se acredita judicialmente la comisión de ese tipo de delitos

pero si no se acredita qué ocurre en estos casos si no se acredita judicialmente

y en otros de reciente actualidad como ibarzaharra que previamente

el iniciar un procedimiento el denunciado se ha visto sometido a un auténtico juicio público y en muchos casos

es que detrás de esos cargos hay personas con sus familias y amigos cuya dignidad y reputación ha sido dañada de manera importante y eso después cuando realmente se acredita que la denuncia no es cierta

no hay una reparación de ese daño causado o acaso alguien del partido popular ha dicho

y esto es lo que es absolutamente indecente e inaceptable

nuestro apoyo y solidaridad por esta campaña orquestada que ha sufrido contra su persona
y como se ha demostrado aunque es duro para quien lo sufre amaitzen joan voy terminando señora presidenta que el tiempo es juez imparcial e independiente

este pueblo es identificado por unos valores y nuestro partido los defiende y trabaja por ellos esfuerzo y honestidad sacrificio y honradez o se ría igual es que usted no conoce estos términos

somos exigentes con nosotros mismos por eso podemos ser exigentes con los demás

aquí existe un control aquí nadie mira para otro lado por más que algunos persistan

yo lo dije en aquel momento y lo reitero ahora la petición de apartar al señor arruebarrena nada tiene que ver con las responsabilidades penales nada

y no se equivoque señor maneiro no le engañó señor pastor es más listo que todo eso sabía perfectamente que era simplemente una maniobra de distracción

llevarlo a la comisión ética y encima ahora dice que es que es responsabilidad del gobierno vasco apartarlo me imagino

a partir de ahora no exigirá nunca por cualquiera que sea la conducta que haga un responsable político un responsable de cualquier empresa o de cualquier departamento del gobierno porque como es responsabilidad del gobierno

el apartarlo o no apartarlo pues no hará ninguna petición más qué ha cambiado pues lo que ha cambiado

el pacto el poder los sillones eso lo tapa todo señor pastor y yo comprendo que

lo que pasa es que a usted le falta todavía para ser como el señor erkoreka en el escapismo de houdini le falta todavía

se ve perfectamente cuál es la justificación del cambio de actitud

se lo dije entonces y se lo digo ahora qué mal

recurrir a todo el a todo vale sobre todo para defender algo que no tiene defensa de verdad

no vale todo y decía usted que no que sabemos leer todos que otro de los delitos aparte del de los viajes que yo le he dicho dice que se podría examinar de inicio el delito del artículo cuatrocientos dieciocho el de que se traspase información pero que por la pena prevista por el legislador no permite entrar a examinar su acreditación por haber transcurrido los plazos de prescripción

que el decreto de fiscalía no es para sacar pecho como le he dicho antes mire sabe lo que pasa se lo dije

es que ustedes se creen caballito blanco es que ustedes ven cosas normales

que se permiten que nosotros no tenemos legitimidad ustedes que hablan de clientelismo político cuando les dan contratos a empresas de familiares de atutxa por más de sesenta y cinco millónes de euros al señor ardanza por más de dos millónes de euros al anterior alcalde de bakio por más de un uno millón de euros al en el que está gotzón bilbao del bbb y el alcalde de basauri por seis millónes de euros a

hablan de puertas giratorias sí pero de las de los demás pero es que no hablan de la colocación del señor inclán del señor ituarte y bueno y ya es que cuando alguien lo hace mal en su partido le premian que no es nuevo que yo cuando estaba en juntas generales de bizkaia a un diputado foral que le tuvieron que cesar luego le nombraron el tribunal económico administrativo que es que en su partido hacerlo mal tiene premio

de la gestión política y la gestión fue nefasta y ahí están los resultados económicos tiene premio y usted qué me quiere decir que todo lo tapan los votos

que alguien comete irregularidades es que si me votan ya mire ustedes tienen dos mantras uno que aquí no hay corrupción y se lo dije el otro día y se lo reitero aquí también

y dos que su gestión es brillante y eso también es un mantra

en absoluto y la gestión del señor arruebarrena es un ejemplo manifiesto de lo que no es una gestión

económicamente y no es buena desde el punto de vista de la ética porque irse de viaje que lo pagaban las empresas y eso viene en el decreto

al ayuntamiento y el ayuntamiento pagaba y no sabía quién iba porque es que en uno de los viajes el de san diego ni tan siquiera se sabía quién había ido al viaje

lo malo es que ustedes lo ven como normal porque ustedes confunden el partido con las instituciones y lo gestionan todo

no las instituciones se tienen que gestionar desde la ética y desde la regularidad y cuando alguien falta a la ética y a la regularidad no se le puede premiar nombrándole en algo tan importante

la irregularidad y la falta de ética no debieran tener premio sino todo lo contrario

buenos días señorías gracias presidenta espero que no haya ningún problema con esta maquinita infernal de votación porque esta proposición va por unanimidad queremos saber de qué se habla en el gobierno no del contenido de sus deliberaciones que son secretas por ley

y que esperamos además que la nueva ley de transparencia obligue a hacer públicas y queremos también tomarle la palabra al gobierno al gobierno que no está pero bueno porque ha realizado ni sé cuantas declaraciones públicas de su compromiso con la transparencia y la explicación de esta iniciativa de esta proposición no de ley es muy sencilla

porque señorías no es raro que el gobierno anuncie cualquier martes una medida que no tiene su traslación en la correspondiente orden económica

y para constatarlo no hay más que repasar la actividad de control de la oposición

y ver que cada semana hay que pedir explicaciones sobre diversos asuntos de los que no se habla

no se soportan sobre ninguna decisión o resolución hasta que el gobierno no tiene a bien trasladarla al boletín oficial en ocasiones varios

como también da cuenta la actividad de la oposición que se adopten decisiones sobre asuntos fuera del orden del día de los que cualquiera de los que nos sentamos en estos escaños

pertinente rueda de prensa normalmente a mayor gloria del consejero de turno así que nosotros hace ya unos meses presentamos esta

con la ingenuidad de pensar que el gobierno nada más tener constancia del registro de esta iniciativa corregiría su opacidad aunque fuera en diferido y lo que ha ocurrido es que no solo no hace público esas órdenes del día es que además ha dejado incluso de remitirlos a la prensa

se supone que trabaja y vende transparencia y finalmente una última gran aportación a estas políticas de puertas abiertas y facilitar información este mismo martes

alentar este debate como queriendo dar palmas a pregonero el gobierno oculta a los periodistas que se molestan en acudir a la rueda de prensa del portavoz una decisión

coinciden en considerar que es relevante que el gobierno pese a lo dicho por múltiples portavoces del partido quien le apoya no ve

que no ve obstáculos en definitiva para reformar la lth que como todos ustedes saben es una propuesta nuestra de los socialistas y ello

y como no cabe otra manera de deducir con el evidente propósito de no comprometer al portavoz

suele estar muy interesado en centrar sus respuestas en criticar a todo el mundo y de evitar algo que pueda suponer una rectificación de su propio partido y esto señorías no

bien porque yo me pregunto esta actitud es la expresión de la apuesta de este gobierno por la transparencia no podemos entender que es

no hace falta ninguna ley para que los ciudadanos sepan qué asuntos se incluyen en el orden del día de los consejos de gobierno solo hacen falta ganas y sobre todo voluntad y si me apuran no haría falta ni una ley bastaría solamente con releerse el código ético

pero sí se le supone el reflejo expreso de una declaración de intenciones porque señorías el código ético en su artículo cinco

obliga a los cargos a ofrecer de forma fidedigna y completa información a la ciudadanía sobre procedimientos informes estudios

y dice taxativamente esta información solo se podrá restringir cuando excepcionalmente epito excepcionalmente así lo prevean las leyes a mayor abundamiento en el artículo trece se establece como único limite

y se apuesta por la publicidad activa procurando

no solo cumplir las obligaciones legales sino aportar un plus de transparencia a sus acciones y a las políticas o actividades de gestión de sus departamentos

lo he dicho muchas veces lo dije también el jueves pasado este gobierno ha heredado del gobierno socialista a parte de la buena costumbre

todas ellas medidas de acercamiento a los ciudadanos y búsqueda de la participación que no están exigidas por ninguna ley y sin embargo este gobierno lleva camino de dejar en herencia comunicaciones

y una serie de mejoras cosméticas en la web oficial que tendenciosamente

ver con mayor claridad lo bien que lo hace el gobierno pero no permite saber las decisiones oficiales que adopta si esa es toda la herencia por si acaso y en su caso tendremos que aceptarlo única y exclusivamente a beneficio de inventario ahora

vamos a ver esas leyes a las que les ha forzado el parlamento nosotros los socialistas hemos adelantado nuestra clara disposición a que tanto la de transparencia como la del sector público

con ritmo con ritmo con alegría porque las consideramos esenciales en la exigencia que nos traslada todos los días la ciudadanía pero ustedes no entran el gobierno no entra con buen pie

a exigencias legales ustedes han correspondido con un cierre del grifo en la información pública a las informaciones críticas con el gobierno responden con la censura en la difusión de esas informaciones

y a la petición compartida por la mayoría de los grupos de esfuerzo de transparencia

con una enmienda de seguir haciendo lo que efectivamente no hacen

se tome enserio ese discurso deben publicar el orden del día de forma accesible para los ciudadanos deben ser

lo hemos dicho otras veces y lo tenemos que repetir hoy si una amplia mayoría de este parlamento cree que el gobierno es oscuro lo más probable es

hoy tenemos aquí este acuerdo hemos llegado a este acuerdo que va a ser aprobado por unanimidad y por tanto agradezco a todos los grupos

con los votos también del grupo que sostiene al gobierno de lo cual nos alegramos profundamente

y a los órdenes del día añadimos la petición de publicidad de asuntos tratados fuera del orden del día y la petición a ver si es posible de que utilicen de que se utilice irekia como canal de comunicación

y no como una herramienta de propaganda si el gobierno empieza por cumplir con este mandato parlamentario y genera una confianza confianza en una apuesta decidida por la transparencia el cauce de comunicación quedará mucho más expedito y por tanto

en este sentido habrá de navegar por aguas mucho menos turbulentas en definitiva hay que predicar con el ejemplo en materia de transparencia porque la transparencia es el marchamo de calidad de los gobiernos abiertos pero además de predicar hace falta

lo que esperamos nada más y muchas gracias eskerrik asko gallastegui

sí gracias presidenta nos parecía bastante razonable

propuesta del grupo socialista ya que es cierto que el gobierno lo que hace es vender a través de su rueda de prensa semanal aquellos temas que le interesan y lo hace de la forma que más le interesa bien es cierto que los periodistas pueden preguntar y buscar matices que el gobierno ha pretendido

pero el gobierno tiene actualmente esa capacidad esa posibilidad de esconder o de no publicitar todo lo que se debate

ha venido haciendo porque es bastante evidente que todos los gobiernos huyen de la transparencia

solamente cosa de este gobierno todos los gobiernos lo que hacen es pretender que haya la mínima transparencia posible y nosotros tenemos que hacer justo lo contrario

intentar que haya la máxima transparencia posible lo mismo hace el gobierno con la web publicando en irekia solo lo que le interesa y de la forma

al gobierno pero hay otros temas que han podido ser tratados y aprobados en el consejo de gobierno de los que no se entera nadie por la sencilla razón de que el portavoz no los comunica en esa rueda de prensa

en la web algunos los que por su carácter legal son obligatorios de publicar en el boletín se conocerán en ese momento de su publicación pero otros no se llegarán a conocer si no quiere el gobierno la propuesta inicial del grupo socialista era un paso

insuficiente ya que pedía que se publique en la web el orden del día del consejo con la idea de conocer los temas que se abordan nada más fácil para dificultar la transparencia que

o espinoso que no quieren que se conozca muchas veces de hecho nada tiene que ver el orden del día del consejo con lo que finalmente llevan los consejeros porque les interesa introducir

por eso propusimos vía enmienda que se publique no solo el orden del día sino el listado completo de todos los temas analizados en cada consejo incluso los que se quedan sobre la mesa y los finalmente aprobados eso sí implicaría un índice elevado de transparencia porque

a recibir el visto bueno del consejo bien esta idea planteada por upyd

se ha incluido alguna otra enmienda planteada por otros grupos y creo que efectivamente ha quedado una transaccional más completa y mejor como decía al principio todos los gobiernos temen la transparencia

de hecho se comprueba si observamos la enmienda planteada por el grupo nacionalistas vascos en fin lo que hace es decir no hay que seguir haciendo lo que ya hacemos y una vez que han visto que

que lo que tenemos que hacer los grupos parlamentarios es vigilar cada vez más y mejor al gobierno qué es lo que hace y tratar de que exista la máxima transparencia posible de hecho

por la transparencia en los tiempos actuales es una de las batallas políticas más importantes que tenemos que enfrentar entre todos gracias

tanto de los posibles excesos que puedan cometer los gobernantes como de información sobre lo que se está realizando en el ámbito institucional para que la sociedad pueda por una parte informarse y por otra tomar parte en dichos debates con las máximas garantías la existencia de un amplio consenso en relación al ámbito que tratamos hoy aquí ayuda a que los planteamientos de unos y de otros puedan ser comunes y cercanos en las demandas al gobierno

firma esta transacción nuestra enmienda como todos ustedes tuvieron la posibilidad de leer asumía la enmienda del grupo proponente y posteriormente

y de cómo creemos por lo menos desde nuestro grupo que debería ser y funcionar dicha herramienta

información y participación ciudadana multiplicando sus contenidos y las posibilidades de participación e interacción directa y atenuando de esa manera su actual toque propagandístico la enmienda transada recoge este punto

a su vez una visión positiva sobre la herramienta de irekia y de su

está claro que aquellos que defendemos irekia como una herramienta cercana a la ciudadanía somos los que apostamos por dicha herramienta como una herramienta útil y que hoy por hoy creemos que está siendo infrautilizada en ningún momento queremos criticar a los y las trabajadoras que realizan su labor en el volcado o en la creación de contenido para irekia

continúe su crecimiento y se convierta no en una ventana de la información del gobierno

entre se involucre y participe de los asuntos públicos gizartearen

muy brevemente porque me iba a sumar con énfasis

del día de todos somos transparentes y hagamos políticas transparentes pero no lo voy a hacer con tanta efusividad porque visto lo visto no

en acta y es que todo el mundo admite uando digo todo el mundo me refiero a todos los países todos los estados modernos que

dos cosas que no son menores por un lado son capaces de apoyar el crecimiento económico porque son sitios que son más transparentes son lugares donde se puede invertir mejor

y una segunda cosa fundamental y es implicar a los ciudadanos en la gobernanza

de los nuevos tiempos políticos es decir algo que algunos vienen a hablar

una parte de la doctrina que viene a hablar de una especie de tercera generación de derechos del hombre el mundo cambia las instituciones cambian una especie de tercera generación

en el derecho a saber el derecho a

como todos ustedes saben por lo tanto la pregunta es quién no está de acuerdo con predicar la transparencia

ineludibles pero claro llevamos

no puede ser que tres años después estemos así algo pasa algo pasa cuando del discurso a los hechos no solo hay un trecho sino que no hay medidas que demuestren que efectivamente

esto de la transparencia y de dotar de herramientas a los ciudadanos

tenemos herramientas sólidas tres años después estamos pidiendo en esta cámara al gobierno que publique las actas

yo puedo entender cierta

rémora poco interés en hacerlo porque la actividad de este gobierno es prácticamente inexistente con lo cual por un lado

y la documentación que comparta con los ciudadanos por lo tanto

es un buen colofón a este punto del acuerdo al que han llegado ustedes

los ciudadanos más informados y el gobierno sin una carga de trabajo añadida porque total para lo que tiene que compartir muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

repetir de nuevo el agradecimiento de los grupos enmendantes y también del no enmandante al apoyo a esta iniciativa y decir que

y también agradezco que el grupo nacionalista haya apoyado esta iniciativa con bastante más entusiasmo

grupo popular pero lo que sí quiero decir es que en definitiva esta iniciativa lo que pretende es fundamentalmente poner deberes al gobierno y

vamos a ver si efectivamente se cumple la prueba de efectividad si efectivamente aquí estamos diciendo que vamos a hacer lo que vamos a hacer

esto es un mandato parlamentario expreso con la de todos los grupos y además con el expreso del grupo que soporta al por lo tanto el gobierno tiene deberes que hacer y en la medida del cumplimiento de esos deberes obviamente todos los cauces de confianza que puedan

en su voluntad de transparencia estarán como digo bastante más

no creo que sea el gobierno el que no hace sus deberes en este sentido tampoco no entiendo

el gobierno manda sus proyectos de ley pero es en el parlamento vasco donde se quedan

la celebración de eventos deportivos de carácter internacional se está consolidando con éxito en las capitales y localidades del país vasco hablamos de una tendencia ganadora que beneficia al deporte beneficia a nuestros deportistas a la economía al turismo

retos y oportunidades como la celebración de la eurocopa dos mil veinte que van a poner a prueba nuestras infraestructuras nuestros servicios

con todo lo que ello implica al más alto nivel la

constituye uno de los sectores con mayor importancia económica y social cualquier evento deportivo se identifica con la generación de ingresos beneficios riqueza para los territorios que lo acogen

por muy modestos y locales que sean y aunque no despierten gran interés de los medios de comunicación son importantes por muchos motivos todos atraen participantes y espectadores pero no estamos hablando del turismo

los partidos de futbito que abnegados padres tenemos que acompañar a nuestros hijos los fines de semana en esta iniciativa no hablamos de eso no hablamos de la promoción del deporte

ni de deporte a nivel local en esta iniciativa nos queremos centrar el grupo popular se ha querido centrar en eventos deportivos de carácter

cada vez más un destino elegido para celebrar estos eventos

consideramos que es un atributo que nos interesa potenciar sabemos que

a un buen número de visitantes de fuera el deporte a todas las escalas y especialmente a nivel internacional se ha convertido en un fenómeno de masas capaz de movilizar no solo a los deportistas sino también aquellos que conforman sus equipos

periodistas y a un sinfín de personas que realizan muchas actividades más allá de la simple presencia en la competición espectáculo

en el país vasco numerosas localidades especialmente las capitales han sido escenario de competiciones deportivas de gran trascendencia social que han supuesto

pero desde el grupo popular pensamos que seguimos teniendo mucho potencial y que nos avala ya una experiencia nada desdeñable a la hora

nuevos eventos a nuestro país la combinación de deporte turismo y negocio es ya discute está claro que en función de la modalidad deportiva en función del tipo de competición de su ámbito geográfico de los participantes

su categoría deportiva de número de espectadores su origen las infraestructuras

son muchos los datos que se podrían aportar para justificar la bondad de esta iniciativa recurriendo a eventos ya realizados como el mundial de baloncesto la final de saltos de gran altura el encuentro internacional de escuelas de rugby

por citar algunos aunque hay muchos más una mención especial merece el hecho

nos han arrojado balances mejores que ese mismo acontecimiento celebrado en ciudades tan importantes como barcelona o madrid es el caso

con un impacto en bilbao de veintiséis coma siete millónes de euros

mientras que en madrid ese impacto fue de veintiuno coma siete

competimos ya a estos efectos en la misma liga que las grandes capitales españolas y europeas

deben ser concebidos y planificados como acontecimientos turísticos sobre todo si hablamos de competiciones de alcance internacional y me refiero a todos los eventos

un congreso nacional de cardiología que va a dejar un impacto de casi cinco millónes de euros en el territorio y con más de

para la sanidad y para la salud pero en la ciudad se recibe también como un acontecimiento turístico como un turismo de eventos de negocios en el caso de los eventos

lo mismo la explicación está clara generan un volumen importante de viajes programas de desarrollo local proyectan la ciudad

las llegadas que se producen las ventas generadas en sectores como restaurantes tiendas hoteles

el empleo derivado de todo ello el desarrollo de capacidades conocimientos y habilidades que se adquieren en la ciudad como consecuencia de la celebración de estos eventos

y la ilusión y orgullo que se despierta siendo son las razones que nos llevan a nuestro grupo a apostar aun más si cabe

un plan de acción junto con las federaciones deportivas de euskadi para traer a nuestras localidades competiciones y eventos deportivos de carácter internacional que contribuyan a fomentar el turismo deportivo y de eventos así como la proyección internacional de nuestras ciudades a esta iniciativa el resto de grupos políticos han presentado sus correspondientes enmiendas y quería comentarlas

porque en el caso de la enmienda nacionalista ni siquiera hace referencia al turismo simplemente se limita que nos parece poco

seguir apoyando a las federaciones para hacer este tipo de celebraciones y eventos en el caso de la enmienda socialista sí que habla

que nos parece muy bien pero es que nuestra iniciativa no iba de eso no iba de deporte

gracias a la organización de eventos deportivos de carácter internacional de eso va la iniciativa y no de otras cosas sin embargo la enmienda de bildu

más al objetivo de lo que pretende esta iniciativa lo que ocurre es que en su seno incluyen algunos

dar pasos para conseguir el reconocimiento de nuestras federaciones es decir introduce el debate más estrictamente político nacionalista

de esta iniciativa es verdad también que luego defenderán una enmienda de transacción

no podría ponerle muchas reservas lo que ocurre es que tenemos demasiado recientes polémicas importantes que tienen mucho que ver con esto

pudo ser también el comportamiento y la utilización política de la eurocopa dos mil veinte por parte

tenemos muchas reservas sobre su actitud real en torno a esta iniciativa aunque es cierto que la enmienda de transacción sí que
estrictamente hablando sería votable gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta y buenas tardes ya a todos efectivamente el tema del deporte vasco la proyección de nuestros deportistas y la preocupación que todos tenemos por intentar incrementar el nivel de turismo con todo lo que ello repercute es una preocupación yo creo que de todos los grupos políticos y que en alguna ocasión ya hemos hablado en sede parlamentaria cuando por centrarme casi en lo que ha dicho la señor ruiz porque la señora ubera ya ha explicado exactamente en qué

en la intervención que ha hecho la señora ruiz respecto a la enmienda presentada por el grupo socialista el grupo socialista leyó

más global o sea de la filosofía de lo que la iniciativa dice estamos absolutamente de acuerdo y cuando el grupo socialista plantea la enmienda una enmienda a la totalidad incluye el tema del deporte vasco lo hace porque cree que era la carencia que tenía la iniciativa original porque está muy bien

que afecta a nuestra comunidad autónoma está muy bien que nos preocupemos de competiciones internacionales lleguen a nuestras capitales y a nuestros pueblos

y de la falta de proyección que hoy en día tienen en el deporte también internacional y digo esto porque en la comisión

hemos asistido a comparecencias parlamentarias en las que los propios deportistas reclaman a través de demandas concretas la situación en la que viven hoy existe una carencia en el apoyo a los deportistas de élite existen faltas de políticas presupuestarias necesitan herramientas que incrementen las posibilidades que tienen de salir de aquí y no solo en temas lo que tiene que ver con temas económicos

digo de nuestras fronteras vascas creo que ellos lo han demandado y por tanto entendíamos que introduciendo las federaciones deportivas

pero nosotros hablábamos de proyección exterior ypromoción interna del deporte vasco era

en la propia comisión y creíamos que incluyendo lo que usted planteaba en su iniciativa original y lo que nosotros creíamos de carencia pues completaba un poco el escenario de la iniciativa original es cierto que cada vez hay más competiciones internacionales en euskadi es verdad y nadie puede negar la recepción que tienen cuando llegan porque es verdad que la sociedad vasca se vuelca

pero es verdad que falta un poco el apoyo a nuestros propios deportistas y que aunque el turismo

que cada vez recibe un mayor número de turistas no solo de turistas que vienen a temas de ocio sino que es una

temas sanitarios temas deportivos temas de abogacía que tuvo vitoria hace unos meses es verdad que nos parecía

por lo tanto creemos que todo lo que redunde en un apoyo al deporte vasco y al deporte no vasco y todo lo que redunde

en parámetros económicos sociales es bueno para euskadi pero creemos que era una forma de poder unir los dos

y creíamos que así se completaba la iniciativa y quizás pues que quedaba mejor

es verdad que inicialmente compartíamos la iniciativa original que usted había planteado pero
creíamos que podría mejorarse nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

con organizar eventos internacionales sino que tenemos que ir más allá de organizar y tenemos que ser ambiciosos para que nuestros deportistas vascos federaciones incluidas

somos conscientes de las dificultades falta de voluntad de agentes implicados pero no nos resistimos a que nuestros deportistas no puedan participar y representar a nuestro pueblo

para demostrar nuestras dotes deportivas el actual gobierno vasco

estos dos temas organización de eventos internacionales y participación vasca en esos eventos internacionales los dos temas por caminos con distintos con problemas distintos a pesar de acusarnos muchas veces de mezclarlo

botatzen duguna nosotros estamos seguros que trabajando de esta forma los resultados serán positivos de hecho como he dicho antes ya hay un calendario para eventos internacionales que se ha puesto aquí esta tarde

que efectivamente en la enmienda nuestra nosotros decíamos seguir apoyando

en todos los eventos que usted ha dicho aquí está el gobierno apoyando por eso decíamos que sigan apoyando en colaboración con federaciones y estamentos e instituciones

señora ubera me emplazaba a que prescindiera de prejuicios y me fuera

y efectivamente atendiendo al contenido voy a votar a favor de la enmienda de transaccional lo mío no son prejuicios es simplemente

el conocimiento de antecedentes y casi estoy sorprendida porque es la primera vez en mi reciente

casi diría porque esto en

mucho más acalorados apasionados y mucho más controvertidos con lo cual ya le digo que no son prejuicios simplemente es pues antecedente en cualquier caso ya digo si me remito al contenido el contenido lo voy a aprobar

no digo accesorios en este caso no he querido poner el protagonismo en ello en el deporte de base que sería objeto de iniciativas protagonistas en sí mismas

aprovechando lo que está ocurriendo en los últimos años por muchos motivos en el país vasco que cada vez nuestras ciudades están siendo destino de

estamos acumulando un saber hacer en estas materias y también se nos está asociando con destino que lo hace bien que somos hospitalarios pues creo que sería bueno aprovechar esa tendencia y

acabemos aprobando el hacer un plan de acción para traer eventos deportivos de carácter internacional de paso que también se van a promocionar valores como la deportividad el respeto el reconcomiendo mutuo

solo había que ver cómo de repente se estimulaba la afición por el baloncesto cuando fue

tiene todas esas consecuencias en cualquier lado

hay maneras de contabilizarlo y tenemos datos entonces aquello que sea ruinoso

pero lo cierto es que hoy por hoy muchos de estos acontecimientos dejan mucha

en algunos casos unas capitales ofrecen en bandeja a otras el hacerlo yo creo que una cierta competitividad no vamos a poder evitar porque hay mucho también mucha competencia entre ciudades pero

debiera liderar entiendo que ya lo va hacer con un plan de acción pues para que

deportistas con la captación de eventos internacionales

se pueda aprovechar pero yo creo que requiere acciones más específicas y que

para poder conseguirlo también es verdad que al margen de todo con lo que se está celebrando este último punto del orden del día no podemos ser

no era perjuicio sino inercia hemos visto que se ha aprovechado eventos deportivos para

a la imagen de la ciudad en cualquier caso me felicito aunque no sea mi iniciativa original la que salga adelante

haga un plan de acción para traer al país vasco eventos deportivos de carácter internacionales gracias eskerrik asko ruiz anderea